señor consejero constatamos con satisfacción que euskadi es un referente internacional en el ámbito de la justicia juvenil así lo han podido comprobar los más de ciento cincuenta profesionales de diferentes países que han participado

en chile los buenos resultados del modelo de justicia juvenil implantado en euskadi hacen del nuestro un ejemplo a seguir a nivel internacional este sistema se empezó a gestar allá por el año noventa y ocho con el primero plan de justicia juvenil y a día de hoy una vez

podemos decir con orgullo que euskadi se sitúa a la vanguardia del estado en materia de reinserción y resocialización de menores lehendakari nuestra más sincera enhorabuena que hacemos también extensible a todos los gobiernos que han participado en la construcción de este sistema

y nos ayudan a conocer mejor la realidad de los menores infractores para tomar las medidas adecuadas

que en muchas ocasiones lleva a identificar menor extranjero con infractor y las cifras estadísticas nos dicen lo contrario

nuestro sistema de justicia juvenil está enfocado a la consecución de unos determinados objetivos yo quisiera poner el acento en dos de estos objetivos el primero

para la consecución de este objetivo cobra un papel fundamental la educación y es que cuanto mejor funcionen todos los departamentos y todas las instituciones que tienen encomendadas funciones y competencias en materia de juventud menor será la necesidad de intervención de la justicia juvenil y el segundo objetivo reinserción y resocialización de menores infractores

en el ámbito de la justicia juvenil todas las penas y medidas que se adopten tienen que estar dirigidas a evitar precisamente que los menores vuelvan a delinquir señor consejero le agradecería que comparta con nosotros los resultados del sistema de justicia juvenil en euskadi

mundu guztiaren aurrean efectivamente una buena parte del éxito y de los buenos resultados

tiene que ver con el seguimiento puntual de las recomendaciones que vienen siendo formuladas en este ámbito por parte del consejo de europa

instancia más avanzada más vanguardista en el ámbito de la justicia juvenil

se preconiza con claridad la conveniencia de sustituir los procesos judiciales fórmulas alternativas de resolución de conflictos como por ejemplo la de la mediación en euskadi en el ámbito de la justicia juvenil hacemos un uso intensivo de la mediación y los resultados están ahí son francamente positivos están poniendo de manifiesto que en más de un ochenta y ocho por ciento de los supuestos

arroja resultados positivos con lo que todo ello tiene de constructivo desde el punto de vista de que constituye una fórmula de autocomposición que deja satisfechos tanto a la víctima como al joven infractor porque son actores de la solución no es un tercero el juez el que propone la solución sino que son los propios actores los que buscan mediante esta fórmula de autocomposición el arreglo y la resolución del conflicto

que conviene reducir al máximo la utilización de medios cerrados para dar respuestas a los jóvenes infractores bueno pues en euskadi podemos

se cumplen en medio cerrado las tres cuartas partes se cumplen en medio abierto y eso constituye

en la reeducación porque continúan viviendo en el ámbito familiar he hablado de la reeducación y es importante enfatizar usted también lo ha hecho la importancia que tiene la reeducación el objetivo resocializador en el ámbito de la justicia juvenil por eso podemos que en el ámbito de la justicia juvenil en euskadi la reincidencia solamente se produce en niveles por debajo del veinte por ciento esto en un seguimiento de cuatro años

los resultados son buenos son mejorables y en ello estamos pero son francamente positivos son fruto de un trabajo intensivo mantenido durante muchos años por el gobierno vasco y es importante destacar sobre todo el objetivo resocializador que es lo que de verdad

por tanto señor casanova el gobierno trabaja de forma constante y de forma proactiva

aún así se dan situaciones de insolvencia incluso de concursos y las actividades del departamento van a tratar de favorecer los acuerdos necesarios para que esa situación de concurso

quiera y el gobierno ayude a que eso se revierta y en caso de que no se pueda hacer se busca un inversor alternativo que tenga un proyecto para rescatar

en su conjunto o parte de él existen otro tipo de empresas las multinacionales algunas de ellas con gran arraigo en el país y trabajando de forma implicada

en este caso el departamento siempre trabaja con la presunción de que

sin embargo cuando las decisiones se toman lejos cuando no se trabaja con la responsabilidad social suficiente el gobierno plantea además un escenario con tres tipos de alternativas

ese tipo de decisión con ajustes pactados además una segunda opción es la de la venta de la actividad y la cesión de inversiones a otro inversor y como tercera opción
un plan de empleo y de formación que permita incentivar la contratación y que el impacto social sea menor esta es la forma de trabajar del gobierno eskerrik asko eskerrik asko

lehendakari el pasado siete de julio tuvo que reconocer en la diputación permanente que no estaba nada satisfecho

aunque usted se empeñara en calificarlo de patrocinio tuvo que admitir aunque fuera torciendo el gesto que se habían cometido errores y se comprometió a corregirlos

pero lo que todos los grupos de esta cámara a excepción del suyo le pidieron al gobierno es que además de evitar en el futuro este tipo de prácticas

en contra de la ley y de las normas de conducta que el propio gobierno se había dado sin embargo cuando mi grupo se ha interesado en saber cómo iba a cumplir el gobierno con este mandato parlamentario nos hemos encontrado con un muro acolchado la respuesta es que la comisión ética encargada de valorar el cumplimiento del código de conducta no entra en la cuestión porque hay un procedimiento penal en curso y esa denuncia penal admitida a trámite es también la excusa

la cantidad que regaló impropiamente a ese grupo de comunicación los jueces lehendakari determinan responsabilidades penales o administrativas de las actuaciones que enjuician

ni para que el gobierno evite la intervención de su comisión de ética

y sobre todo los mandatos de este parlamento por eso le pregunto cómo y cuándo va a hacer usted cumplir los mandatos de esta cámara del pasado siete de julio

comenzar diciendo que el gobierno está actuando con absoluta transparencia y nuestro compromiso es cumplir tanto las propuestas o las iniciativas presentadas directamente por mí como también los acuerdos adoptados en esta cámara el día siete de julio

lo que dije y es que el gobierno ha asumido con humildad y claridad ámbitos de la gestión de determinados patrocinios que pueden ser mejorados lo dije y así lo estamos haciendo estamos mejorando la gestión y actuando con transparencia y la prueba está en manos de este parlamento al que hemos remitido toda la documentación correspondiente a los nueve primeros meses del año en concreto en relación a lo qué es

el gobierno solicitó un dictamen de la comisión ética no para lo que es la recuperación del dinero contratado sino para lo que pudieran ser

ética dictaminó o determinó que la actuación en materia de publicidad institucional se ha ajustado a los requerimientos del código ético

le digo que respetando este acuerdo hemos solicitado para este asunto particularmente un informe de legalidad y le leo textualmente por qué lo solicitamos para determinar si en la situación actual es viable legalmente cumplir el acuerdo aprobado por el parlamento y demandar la devolución del dinero público

que dice así a fecha de hoy es de todo punto prematuro considerar que los contratos de patrocinio controvertidos sean nulos de pleno derecho cuando ni siquiera se ha planteado imputación en el seno de las diligencias previas que se siguen ante la jurisdicción penal ni se ha detectado tampoco motivo de anulabilidad ni lesividad los contratos deben entenderse eficaces

por parte de la administración una pretensión devolutoria de los pagos efectuados en cumplimiento de servicios efectivamente prestados

los acuerdos del parlamento ahora bien en esta materia concreta

en virtud de hacerlo con rigor no podemos actuar de forma unilateral desoyendo este informe de legalidad eskerrik asko

bien señor lehendakari me ha dado usted alguna respuesta y creo que también algunas excusas en el asunto de la compraventa de información pagada con el grupo de comunicación afín a su partido
estamos ante lo que técnicamente se puede considerar casi ayudas de estado

fuera del reparto general de la publicidad institucional del gobierno abierta a todos con el añadido que se dan contra lo que establece la propia ley de publicidad y en abierta contradicción

no solamente de pedir informes de legalidad sino de asumir compromisos y responsabilidades políticas lehendakari de eso hablamos y de eso hablaba también la resolución parlamentaria

porque no fueron accesibles para el resto de periódicos y emisoras de radio de euskadi otra cosa es que esos otros medios

publicar como información lo que solo era propaganda política del gobierno y además lo acabo de decir esas ayudas son como mínimo irregulares no sigan enredándose en el concepto de patrocinio usted ha vuelto a insistir permanentemente en la palabra patrocinio

no se patrocinan informaciones pagadas y cuando se hace utilizando dinero público como es el caso y favoreciendo unos medios por encima de otros

se queda pequeño correspondería más bien hablar de ayudas

en cualquier caso lehendakari agradezco el gesto de que al menos hayan intentado poner en marcha la primera parte de la resolución de pedir el informe de legalidad pero le pido que vaya un poco más allá que asuma aquí en este parlamento el compromiso político de hacer todo lo posible para recuperar esas ayudas ayudas que por cierto son de cientos de miles de euros

tiene recogida en el presupuesto y que hoy por hoy todavía es claramente insuficiente

mire señor pastor usted ha hecho determinadas consideraciones sobre ayudas de estado

espero que con el tiempo usted mismo pueda corregir también las cuestiones referidas a las cuantías a las que ha hecho referencia ha mencionada nuevamente la asunción de responsabilidades yo le he respondido con lo que fue

y del código ético y de la comisión de ética pública le he citado también cuál fue la resolución de la comisión de ética pública en cualquier caso la pregunta está centrada en lo que es la recuperación del dinero de los contratos yo le he dicho en mi primera intervención también cómo este gobierno actúa con absoluto rigor

por la propia diputación permanente en la sesión del siete de julio pasado y el gobierno no se escuda en el procedimiento judicial abierto todo lo contrario toda la documentación que ha sido requerida por los tribunales y recuerdo que esta es una cuestión

dinero público y el informe de legalidad señala con claridad que en este momento no podemos solicitar su devolución y actuaremos con absoluto rigor

porque había que mantener el estado de bienestar social hoy

o establecer criterios para recaudar más dinero siempre a costa de los ciudadanos también la excusa siempre es mantener el estado de bienestar social nosotros lo que vemos es que este gobierno lo que no hace es controlar el gasto corriente no vemos que haga ajustes vemos que se incrementa el gasto corriente

le voy a citar un par de ejemplos usted conoce como todos conocemos el desbarajuste de lanbide y además hay consejeros que tienen

tarjetas sanitarias para todos los ilegales de la unión europea y

hay que subir los impuestos a los ciudadanos para mantener todo eso y por eso la pregunta que le hacemos al señor consejero es qué criterios está utilizando este gobierno
o qué impuestos plantean subir o crear eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko

muchas gracias señora presidenta señor consejero ya sé lo que viene en los presupuestos

a mí lo que me preocupa es cuando el lehendakari dice que hay que reflexionar sobre si los impuestos actuales garantizan las prestaciones sociales porque si el señor lehendakari nos está planteando eso tengo que colegir solo caben dos interpretaciones una que hay que subirlas o dos

las prestaciones sociales yo solo sé que en aras a esta garantía

el siete por ciento este año como el año pasado la rgi digo el de los vascos qué veotambién y se lo dije

que lo planteamos el otro día en la comisión de economía cuando usted trajo y presentó el presupuesto hay otras formas

además de subir impuestos que generalmente no se traducen en mayores subidas de recaudación hay otra forma que es crear empleo

pero esa prioridad en esos presupuestos que usted nos decía a nosotros no la vemos no la vemos en este presupuesto dónde está la inversión en este presupuesto

incluso en etb que es una máquina de gastar dinero

compra de productos fuera nosotros qué le estamos planteando a usted

fije las prioridades y se lo llevamos diciendo desde hace un año en la creación de empleo inviertan

inversión ayuda a las empresas ayuda a los emprendedores

no hay problemas para mantener y financiar el estado de bienestar social

en ningún sitio del mundo ahora bien si aquí no vamos a hacer un control exhaustivo del gasto interno vamos a seguir incrementando el gasto interno cada vez vamos a necesitar más recursos pero no creamos empleo y además no es una de las prioridades del presupuesto que ustedes nos han traído pues mal vamos mal vamos

no me ha contestado por que usted me dice el presupuesto de ingresos

pero yo no le he preguntado por eso también sé que tenemos ahora capacidades en cinco nuevos impuestos

este año y por lo tanto más recaudación de esos impuestos pero el tema no es ese el tema es la política de este gobierno va a seguir siendo
incrementamos el gasto corriente y los eskerrik asko damborenea jauna gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

gracias presidenta buenos días señor lehendakari hay que

para ello hacen falta medidas de transparencia y de lucha contra la corrupción política la justicia en españa está en manos de los partidos políticos que

y la parasitan hay que acabar con esta politización para

independiente además hay que despolitizar y profesionalizar los tribunales de cuentas los órganos de control

y ahí voy las radios y las televisiones públicas porque profesionalizar y despolitizar los medios públicos de comunicación también es una medida de regeneración de la democracia los partidos en el gobierno siempre han querido controlar los medios públicos de comunicación creo que esto lo sabemos todos

del país ejemplos evidentes la radio televisión española

canal sur y tantos otros históricamente siempre ha sido así los gobiernos y los partidos políticos intentan instrumentalizar las televisiones y las radios públicas para ponerlas a su servicio frente a esto lo que nosotros defendemos son unos medios públicos de comunicación que sean serios que sean rigurosos

que sean objetivos plurales y que sean también críticos con el gobierno la señora iturbe se convirtió en directora general de e i te be gracias a un acuerdo

y el partido socialista de euskadi y sin haber presentado ni explicado su programa año y medio después nadie duda del sectarismo

ni de que ha puesto a e i te be al servicio del partido nacionalista vasco

así lo hemos dicho ayer mismo la última vez todos los grupos sin excepción de la oposición año y medio después todos los grupos de la oposición consideramos evidente que la señora iturbe está

y al servicio del partido nacionalista vasco ante estos hechos que son objetivos le preguntamos si apoya el mantenimiento en su puesto de la actual directora general de e i te be

esta cámara efectivamente eligió a la directora general de e i te be hace menos de dos años y ayer sí ayer mismo debatimos sobre su hipotético cese y el parlamento se pronunció y yo respeto esta decisión y aún tomando en cuenta las consideraciones realizadas kontutan hartzen dut atzo egindako iradokizunak el balance de su gestión profesional ha sido positivo

a las críticas que también para con el gobierno han de ser desde una televisión pública porque esto de las críticas para con el gobierno particularmente daría para mucho

en momentos de menor disposición de recursos está consiguiendo mantener los resultados señor maneiro la audiencia de e i te be

tienen expectativas positivas y me limito a lo que es la gestión profesional esto solo se logra con un servicio público profesional

y esta gestión por lo tanto señor maneiro cuenta con nuestro respaldo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí señor lehendakari yo no he hablado para nada de audiencia yo lo que le digo y creo que es un hecho evidente y usted lo conoce es que

apoya a la directora general de e i te be esta es la realidad esto es lo que se ha evidenciado en las últimas semanas esto es todo lo que han dicho los demás grupos en las últimas

informativa se ha hablado de que e i te be a día de hoy es un medio de propaganda se ha hablado de adoctrinamiento se ha dicho que e i te be lo que hace es nodo a favor del gobierno y del partido nacionalista vasco se ha dicho por parte de todos los grupos de un modo o de otro cada uno con sus diferencias que es un

se ha hablado de sectarismo y se ha insistido por parte de todos los grupos que e i te be se ha convertido en un instrumento al servicio del partido nacionalista y al servicio del gobierno vasco creo que este es un hecho evidente es evidente que únicamente el partido nacionalista vaso apoya a la señora iturbe y esto no puede continuar así por lo tanto en nuestra opinión por sectarismo

la señora iturbe es abandonar cuanto antes su puesto y esto creo que debería reconocerlo el gobierno porque ya digo no tiene apoyo suficiente a día de hoy

iturbe cuenta con el apoyo del partido nacionalista vasco sí objetivo que la tendencia de las informaciones sea sectaria subjetivo

que hay mucha tendencia también en contra de este gobierno en los informativos de e i te be tan subjetivo dejémoslo ahí yo me aferro a lo que es el rigor de la gestión profesional

al valorar su actuación usted emite opiniones y yo le aporto datos significativos señor maneiro usted no quiere hablar de audiencia yo sí quiero hablar

era el trece por ciento su previsión es cerrar este año con el trece por ciento las emisoras de radio tenían cuatrocientos noventa mil oyentes diarios en dos mil doce

la previsión es que cierren este año en primera posición la plantilla de e i te be en dos mil doce era de novecientos setenta y nueve personas este año será de novecientos setenta y nueve personas

y de hecho el presupuesto de e i te be en dos mil doce fue de ciento treinta y nueve millónes y hoy es de ciento veintidós y por lo tanto con un doce por ciento y la misma plantilla su previsión es

y esto solo se puede conseguir con una dirección profesional con experiencia en el sector y comprometida con el futuro de e i te be y la directora general y su equipo merecen nuestro respaldo mejores resultados con menores recursos es la ecuación de la buena gestión profesional y esto es

sí gracias presidenta señor lehendakari no hace demasiado el pasado día doce de junio

defendió en este pleno una iniciativa parlamentaria que proponía exactamente lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno de españa a que por un lado en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestosde aforamiento previstos en la constitución sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias y por otro lado sin prejuicio del anterior y mientras ese proceso de revisión constitucional se produce en el plazo máximo de seis meses impulse toda la reformas legales necesarias a fin de suprimir en el ámbito

que han proliferado en distintas leyes en los últimos años proponíamos también que este parlamento instara al gobierno vasco y se comprometiera él mismo a impulsar

todas las reformas legales que sean necesarias con el objetivo de eliminar todos los supuestos de aforamiento existentes actualmente en euskadi sometiendo a revisión en su conjunto

y a las diputaciones forales a impulsar todas las reformas y normativas que sean necesarias con el objetivo de eliminar los supuestos de aforamiento previstos en el ámbito de

no recibió el apoyo de ningún otro grupo parlamentario y por tanto decayó del mismo modo o parecido que iniciativas semejantes decayeron antes en otros parlamentos y en concreto en el propio congreso de los diputados en aquella ocasión cuando defendimos la supresión

en fin todos los grupos criticaron contundentemente la propuesta de upyd y consideraron innecesaria la idea de suprimir los aforamientos existentes en españa ese mismo día doce de junio se aprobó la enmienda presentada por el grupo socialista votada por el grupo proponente y también por upyd que decía lo siguiente el parlamento vasco considera procedente abrir un proceso de examen reflexión y adecuación del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites una enmienda en nuestra opinión claramente insuficiente pero algo más que nada esto de al menos considerar procedente abrir un proceso de examen y reflexión sobre la cuestión es curioso porque después de aquello y después de que el grupo popular también en el congreso de los diputados nos llamara de todo por proponer esta iniciativa

sustentado por el grupo parlamentario que vilipendió la propuesta de upyd planteada en el congreso afirmaba en una entrevista periodística lo siguiente proponemos pasar

a veintidós admitiendo de ese modo al menos parte de los planteamientos expuestos por nuestro partido político unos pocos meses antes y que el mismo ministro criticó

nacional se han mostrado ahora sí dispuestos a abordar la cuestión como una de las medidas de regeneración democrática indispensables para recuperar la confianza de los ciudadanos consideramos apropiado volver a traer el asunto a debate y preguntarle a usted sobre esta cuestión por eso le preguntamos

piensa tomar su gobierno que estaría dispuesto a impulsar para desde euskadi eliminar la anacrónica institución del en nuestra opinión no debería haber ni un solo aforado ni en euskadi ni en el conjunto de españa cero aforados ese sería el objetivo de

implica alterar las reglas de competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas quienes tienen derecho a ser encausadas y juzgadas

el aforamiento hoy en día como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y asociaciones judiciales supone un verdadero anacronismo no tiene ningún sentido que se mantengan esta institución en el siglo se ha pretendido justificar alegando que las elevadas funciones de los beneficiarios de tales prerrogativas exigen protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder

pero la verdad es que tal argumento resulta incomprensible en el día de hoy en un estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentalización política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales la institución del aforamiento ha sufrido una extraordinaria expansión

deban ser conocidos por un órgano judicial diferente al habitual el aforamiento supone por lo tanto una excepción evidente al principio de igualdad una diferenciación una distinción de trato porque precisamente los altos tribunales del estado como el tribunal supremo o los tribunales superiores de justicia son los más susceptibles de politización habida cuenta de que en el nombramiento de sus magistrados interviene directamente

del poder judicial a cuyos miembros nombran a su vez

mediante un calculado sistema de reparto de cuotas además el aforamiento conlleva que tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando

deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente perdiendo así el caso la figura del aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y algo que nos parece ciertamente importante en los tiempos

de que la justicia no es igual para todos hay una mayoría inmensa de ciudadanos que a día de hoy lo que pretende es que los partidos políticos impulsemos medidas para regenerar la democracia también aquí en euskadi y desde luego hay una inmensa mayoría de ciudadanos que a día de hoy que esta institución del aforamiento desaparezca de tal forma que no haya un solo aforado y que todos los ciudadanos seamos tratados igual

ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa como la pérdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia también por ello hay que suprimir el aforamiento en españa por lo tanto existen más de diez mil aforados

los parlamentarios autonómicos presidentes autonómicos y miembros del gobierno regional hay por lo tanto miles de aforados

y otros a las audiencias provinciales pero todos con idéntico anacrónico privilegio los más perjudiciales son aquellos que afectan a los cargos de designación política porque se percibe por la ciudadanía como un privilegio creado

por corrupción política así se percibe por parte de la ciudadanía miremos que es lo que pasa a nuestro alrededor

e italia no tienen más que un aforado francia tiene

aforados en alemania no hay ningún aforado en el reino unido no hay ningún aforado en estados unidos no hay ningún aforado que los ciudadanos perciban que los partidos políticos queremos cambiar alguna de las cosas que les preocupa

por lo tanto hay razones evidentes para dar pasos cada uno en su ámbito competencial para eliminar esta institución hay razones suficientes

ante la ley todos los ciudadanos debemos recibir el mismo trato el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad una diferenciación y una distinción

en lugar de los tribunales ordinarios el aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y una sensación en la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos a los aforados se nos trata de modo distinto que al resto de los ciudadanos se trata por lo tanto de defender

se trata por lo tanto de acabar con todos los privilegios existentes a día de hoy ya digo nuestra posición es clara y la llevamos años defendiendo

lo seguiremos haciendo y creo por las declaraciones de determinados miembros de algunos partidos políticos que podemos alcanzar más pronto que tarde ese objetivo acabar con todos los privilegios y nuestro objetivo ya digo que es

ni en euskadi haya ni un solo aforado y por lo tanto le pregunto por lo que piensa usted sobre la cuestión y si estaría dispuesto a impulsar medidas

efectivamente ha hecho usted un repaso completo de lo que supone la figura jurídica del aforamiento su tratamiento legal y el

política y mediática más moderna el aforamiento constituye usted lo ha hecho notar una figura jurídica propia del ámbito del derecho público en virtud de la cual determinadas personas en función de los cargos que ocupan o de las funciones que desempeñan

por el juez de primera instancia sino lo van a ser por un tribunal superior que puede ser el supremo el tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma correspondiente o en su caso también en algunos casos de aforamiento la audiencia provincial correspondiente

arraigada en el derecho público y procesal del estado español que apenas tiene presencia en otros

en otro estados y sobre la que se ha escrito muchísimo

con respecto al aforado el régimen del aforamiento tiene efectos positivos y tiene efectos negativos tiene efectos positivos en la medida en que esto no lo digo yo hay una larga doctrina del tribunal constitucional que ha postulado estos planteamientos y

los efectos positivos son que a través del aforamiento se pretende

una determinada independencia institucional hacer que determinados cargos de determinadas responsabilidades públicas queden al margen o puedan sustraerse al efecto perturbador que pueda producir una utilización torticera de la judicatura para atacarlos o para impedir su actuación insisto

el tribunal constitucional en numerosas ocasiones y forma parte además de la reflexión que la doctrina jurídica los procesalistas

en su doctrina es tributario de la presencia en su seno durante muchos años de un catedrático de derecho procesal

de algunas de las aportaciones que se han hecho a la doctrina del tribunal constitucional en relación con este asunto

ha apuntado algunas patologías

la sensación de la ciudadanía es que el aforamiento produce

en la tramitación de algunos procedimientos y la convicción o la sospecha de que las personas aforadas son objeto de un tratamiento privilegiado por parte de los jueces

reconduzca la competencia objetiva a tribunales superiores cuya composición

es adoptada o es acordada por el consejo general del poder judicial que tiene una designación

designados por el congreso por el senado en fin a través de los procedimientos establecidos en la ley bien

la persona que se acoge al mismo el

la persona aforada carece del derecho a la segunda instancia

expresamente reconocido en la constitución el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a los recursos pero el derecho a los recursos que están recogidos en la ley

pues es un derecho que difícilmente se puede invocar porque es un derecho de configuración legal sin embargo se puede decir que el derecho a la segunda instancia en el ámbito penal forma parte de nuestro ordenamiento jurídico a través de la previsión contenida

en el apartado segundo del artículo diez de la constitución cuando dice que las previsiones de la constitución relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas se interpretarán con arreglo a los pactos

convenios y pactos internacionales suscritos sobre la materia en los que el derecho a la doble instancia penal aparece expresamente recogido podríamos citar el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el convenio europeode derechos humanos

ambos han sido suscritos por el estado español y ambos tienen por tanto una presencia efectiva en el ordenamiento jurídico español con independencia de lo que al respecto pueda establecer el ordenamiento

de la ley orgánica del poder judicial que tuvo lugar el año dos mil tres tendió a generalizar la segunda instancia en el ámbito penal

un recurso de apelación para las sentencias penales de las audiencias provinciales ante los tribunales superiores de justicia y para las sentencias de contenido penal de la audiencia nacional ante el tribunal supremo hay una tendencia en ese sentido pero es cierto que

el sistema del aforamiento impide que la persona aforada pueda acogerse a esta segunda instancia y es un obstáculo para la persona aforada

especiales para quien sin ser aforada es una persona que es arrastrada por la figura del aforado al conocimiento de la causa penal en la que pudiera estar implicado como consecuencia del aforamiento y de la atribución de la alteración de las reglas de atribución de competencia objetiva de los tribunales

ya hay resoluciones del comité de derechos humanos de las naciones unidas que están poniendo de manifiesto las perturbaciones que el régimen de aforamiento plantea en relación con el derecho a la segunda instancia penal

dictámenes que no son jurídicamente vinculantes hasta la fecha y en la medida en que el legislador no adopte medidas más drásticas alterando o suprimiendo sencillamente las previsiones jurídicas que contemplan el aforamiento pues esas cautelas esas observaciones del comité de derechos humanos

el problema es que el aforamiento hoy por hoy está contemplado en normas jurídicas

del gobierno no son por tanto previsiones que puedan ser

estamos hablando de la ley orgánica del poder judicial estamos hablando de los estatutos de autonomía y estamos hablando incluso de la ley de fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado

supuestos específicos de aforamiento ninguna de estas normas que acabo de citar puede ser modificada por el gobierno y el impulso para su modificación podría ser

de esta cámara que tiene iniciativa legislativa con presentar una proposición de ley que se tramite en la cámara como proposición de ley que plantea una iniciativa autonómica para reformar la constitución o el estatuto de autonomía o la ley orgánica del poder judicial pues podría hacerse perfectamente

a una iniciativa que usted presentó y defendió aquí en la cámara allá por el mes de junio de este mismo año una iniciativa en la que se planteaba la adopción de medidas tendentes a la supresión del aforamiento y a la modificación o a la derogación de las normas que la configuran que la prevén y configuran

figura jurídica pero esa iniciativa no prosperó y si no prosperó no fue por el gobierno sino porque la cámara no le prestó apoyo sin embargo usted se sumó formulada por otro grupo parlamentario en la que lo que se planteaba no era directamente derogar esas normas sino que se planteaba el examen reflexión y adecuación iniciar un proceso de reflexión un proceso de reflexión al que lógicamente el gobierno no se opone y lo que hoy estamos haciendo este intercambio de opiniones puede formar parte de ese proceso de reflexión

que la iniciativa que en relación con el borrador de ley orgánica del poder judicial adoptó el gobierno central a impulsos

en el que se suprimía la figura del aforamiento para un amplio elenco de los cargos públicos que venían estando aforados y que siguen estando aforados con la ley orgánica del poder judicial vigente actualmente

nosotros desde el gobierno vasco hicimos muchísimas alegaciones a ese proyecto de ley a ese anteproyecto

esa es la posición de este gobierno no defendemos el aforamiento en absoluto independientemente

y que yo he pronunciado aquí de aspectos positivos y negativos del mismo el gobierno por tanto no se opone el problema es que no depende del gobierno la adopción de medidas jurídicas que supongan esa supresión eskerrik asko

lo cierto es que en los últimos tiempos están cambiando algunas cosas

upyd se quedaba permanentemente solo defendiendo determinadas medidas de lucha contra la corrupción política o medidas

viendo que están en peligro de seguir vivos

prometen nuevas medidas de regeneración justo aquellas medidas que votaron en contra no hace demasiados meses este es un ejemplo de esto

en absoluta soledad la supresión de todos los aforamientos y todos los grupos de la oposición de un modo u otro lo que hicieron fue defender la institución del aforamiento

o vamos a reflexionar sino que lo que dijeron expresamente es que había que mantener esta figura esto básicamente fue lo que dijeron

de mantener esa postura porque ya digo que los tiempos están cambiando y hay una mayoría de ciudadanos que están hartos de determinados privilegios que mantienen

para impulsar todas las medidas que sean necesarias medidas legales impulsadas por este gobierno y también por el gobierno de españa para conseguir ese objetivo de que no exista ni un solo aforado que no haya ni un solo aforado entonces podremos escuchar de nuevo a los portavoces de los grupos

definitiva sobre la cuestión efectivamente el señor gallardón después de llamarnos demagogos y populistas por pretender la reducción de número de aforados recientemente dijo que

a veintidós y lo defendió como una medida de regeneración de la democracia después de insultar a upyd por proponerlo

un pacto para reducir los aforados pedro sánchez apoya la iniciativa del grupo socialista que meses antes había votado en contra de la iniciativa por upyd lo cierto es que hay muchos expertos en la materia muchos juristas que en los últimos tiempos han venido diciendo cosas muy interesantes

señor esparza decía que el aforamiento no respeta el principio básico de igualdad o

eligen a quienes les van a investigar y enjuiciar y añadía que el aforamiento es legal

upyd quien plantea la supresión de los aforamientos sino que incluso expertos juristas lo han venido defendiendo durante los últimos meses la presión social está haciendo que

están cambiando al menos de palabra esa posición antes se oponían todos a la supresión del aforamiento y ahora parece que están diciendo cosas diferentes veremos a ver

el debate de la moción que vamos a presentar en breve para debatir de nuevo esta cuestión de la misma forma que vamos a llevar también el debate al congreso de los diputados a ver quién tiene el rostro de seguir defendiendo la institución del aforamiento porque evidentemente en caso de que sea así

a los ciudadanos en todo caso nuestra propuesta va a ser en positivo va a ser para seguir o empezar a dar pasos para

esta figura por las razones que he dado antes porque todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley porque todos los ciudadanos debemos recibir el mismo trato porque el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad una diferenciación

del trato en fin por todas las razones que he dado antes porque si observamos qué es lo que se hace en nuestro entorno vemos que en los principales países democráticos no hay aforados o hay un aforado o hay dos aforados o hay diez aforados como máximo y en españa tenemos casi y en euskadi cuatrocientos y esto lógicamente hay que cambiar

una moción para instar al gobierno vasco y también instar al gobierno de españa los pasos necesarios para acabar definitivamente con esta anacrónica institución de sabios es cambiar es posible que algunos partidos políticos cambien y reconozcan que hay que dar este paso ojalá sea así nosotros bienvenida a esos grupos que pretendan sumarse a upyd en la lucha por la regeneración de la democracia y en contra de todas las corrupciones gracias

comentaba usted conmigo que ha planteado una interpelación cuanto menos heterodoxa

la plantea como interpelación en el sentido de que pide cuentas al gobierno sobre lo que el gobierno tiene previsto hacer en relación con este asunto

sirviéndose para eso de la moción que será consecuencia de la interpelación pero no es algo que el gobierno pueda

que el gobierno en esta materia con una ventaja una ventaja inmensa además cualquier proyecto del gobierno

para impulsar reformas sea en la constitución sea en la ley orgánica del poder judicial sea en

debería superar un procedimiento riguroso serio plagado de informes que no permitiría que la iniciativa estuviera aquí antes de

la registra e inmediatamente al día siguiente puede estar debatiéndose aquí o sea que si la cosa tiene prisa realmente pues no tenía mucho sentido que usted instara al gobierno a que hiciera algo al respecto con que usted la registre

quién para defender a ruiz gallardón que ya se defiende él solo no pero

tenido la ocasión de leer efectivamente la interpelación que presentaron ustedes en madrid

del aforamiento y he leído con interés las afirmaciones que hacía

unas alegaciones que usted considera que ahí les insultaban porque les calificaban de demagógicos a mí más que insultar me parecía que utilizaban mucho la ironía porque me ha llamado la atención una observación que hacía precisamente en relación con el curriculum personal de rosa díez que era la que defendía la iniciativa porque

jamás le he oído defender nada en relación con el aforamiento jamás

por ser parlamentaria vasca luego por ser consejera del país vasco luego por ser europarlamentaria y ahora por ser diputada en el congreso de los diputados yo creo que él le decía que ella era después de alfonso guerra la que más años llevaba aforada ahora que se retira alfonso guerra seguramente será la que más por tanto esa distinción

se tiene en el partido presuntamente nuevo a una persona que lleva

de permanencia en el estamento político y tiene y ha disfrutado de privilegios que ahora

aspecto curioso pero en cualquier caso en fin son observaciones que hago al hilo de sus comentarios porque ciertamente

de la interpelación cuando usted registre la moción ya se suscitará el debate oportuno en el parlamento y ya serán los grupos parlamentarios los que

sobre el particular yo sí le puedo decir que por lo que al gobierno respecta la propuesta que vino de reforma del consejo de la ley orgánica del poder judicial procedente del ministerio de justicia incluía una supresión amplísima

de las situaciones de aforamiento actuales y el gobierno vasco que hizo muchas alegaciones a ese anteproyecto a ese aspecto no hizo ninguna alegación por tanto

y que estamos por la línea de suprimir los aforamientos porque no creemos primero que

tradicionalmente se ha defendido como de positivo del aforamiento no lo es tal

numerosas los efectos negativos que está produciendo y la percepción social es francamente negativa y sin embargo además tiene un efecto perturbador clarísimo en relación con la

que es una garantía que suprime de hecho a los aforados y a las personas que no siendo aforadas pues se sienten arrastradas por las personas aforadas como consecuencia de estar participando o estar implicadas en el mismo procedimiento penal

sí gracias presidenta el objetivo de esta interpelación es conocer cuáles son las medidas que defendería el gobierno vasco para luchar contra la lacra de la corrupción política

a través de la correspondiente moción que seguramente planteemos para volver nuevamente a instar a este gobierno y al gobierno de españa y a todos los gobiernos que sean necesarios a

para luchar contra la corrupción

viendo las cosas que están ocurriendo en españa a lo largo de los últimos meses y a lo largo de los últimos años y de las cosas que también están ocurriendo

lo cierto es que si miramos a nuestro alrededor podemos decir claramente que la corrupción política en estos momentos está institucionalizada en españa que los ciudadanos

denominar como un crimen organizado un latrocinio continuado y un asalto a los dineros públicos permitido durante años por

tradicionales partido popular partido socialista y los partidos periféricos que han sustentado ese bipartidismo hoy afortunadamente se desploma los ciudadanos están hartos por lo tanto de todas las prácticas que se han llevado a cabo y que han sido permitidas por esos grandes partidos políticas tradicionales y por lo tanto reclaman medidas contundentes contra la corrupción política es evidente que sobre todo plantean dos medidas que habría que aplicar ya primera medida que los corruptos vayan a la cárcel

devuelvan el dinero creo que podríamos resumir así los deseos de la ciudadanía en relación con este latrocinio y este crimen organizado puesto en marcha por algunos conocemos las cosas que han venido ocurriendo

los sobres del partido popular la caja b del partido popular el caso pujol

las tarjetas opacas en fin tantas y tantas cosas lo penúltimo que hemos conocido ha sido en fin esa especie de crimen organizado y puesto en marcha presuntamente nada más y nada menos que por el número dos de esperanza aguirre en madrid consecuencia de lo cual

de dinero público evidente en fin son muchísimos casos y estos casos no se producen porque sí sino que se producen porque efectivamente los partidos

no han movido un dedo durante largos años para acabar con esta lacra y eso que upyd durante todos estos años ha planteado medidas muy contundentes de lucha contra la corrupción política sin ir más lejos ya en dos mil siete en cuanto upyd nace señalamos el problema y décimos que la corrupción política en españa es uno de los grandes problemas existentes cuando décimos esto

vienen a negar los hechos dicen que no es para tanto y que son casos aislados hemos planteado durante todos estos años una serie de

a favor de la transparencia interna como la publicación de las cuentas del partido o

de los cargos públicos hemos puesto en marcha sin que nadie nos obligara a ello iniciativas de control interno como la aplicación obligatoria de un código ético y de buenas prácticas

de upyd hemos planteado iniciativas del tipo primarias obligatorias para todos los partidos políticos o listas desbloqueadas como forma también de regenerar la democracia nos hemos cansado de defender en el congreso de los diputados

es un hecho evidente que hoy la justicia en españa está tomada por los partidos políticos tradicionales que se la reparten por cuotas hemos defendido permanente la profesionalización de la justicia y no s hemos quedado solos

hemos defendido iniciativas como una ley de transparencia digna de tal nombre que se pudiera homologar a lo que ya existe en países de nuestro entorno hemos defendido iniciativas para despolitizar los principales órganos reguladores y de control que ha fallado estrepitosamente durante años porque también tomados por los partidos políticos tradicionales hemos defendido defendimos en su momento

los órganos de gobierno de las cajas de ahorros politización que luego tuvo las consecuencias que tuvo muchas de ellas se hundieron como consecuencia de esa politización

innumerables iniciativas hemos planteado iniciativas para profesionalizar la administración para reducir los cargos a dedo y para acabar con el enchufismo

defendido y nos hemos quedado también permanentemente solos iniciativas para que los imputados por corrupción política no pudieran ir en listas electorales durante siete años y permanentemente el partido popular y el partido socialista se han opuesto a ya digo iniciativas perfectamente razonables razonadas

hemos planteado también iniciativas para modificar el código penal para que la financiación de los partidos políticos sea delito todavía no lo es o para que sea delito también

lo hemos planteado y todavía esto no se cambia bien durante todo este tiempo ya digo que todas estas iniciativas han sido rechazadas por los grandes partidos políticos incluso aquí también se han negado

de los aforamientos o como la profesionalización del tribunal vasco de cuentas públicas más allá de que por ejemplo esta medida de la profesionalización de los tribunales de cuentas

que quiere poner en marcha el partido socialista a pesar de que hace pocos meses votó en contra en fin

contra la corrupción política esto no ha sido

tradicionales se han negado y han votado permanentemente en contra hemos tenido que recurrir a querellas más de veinte querellas planteadas por upyd la querella a bankia la querella de las preferentes la querella de caja segovia

y tanta otras como forma de luchar contra la corrupción política ahora

con lagrimas en los ojos hacen ruedas de prensa para pedir perdón

y si no se ha puesto antes lo que hay que hacer es ponerlas en marcha y es lo que nosotros vamos a proponer con nuestra moción no vale decir que bárcenas es un sinvergüenza no vale decir que estamos en contra de todas las corrupciones no basta poner cara de pena en las ruedas de prensa diciendo que esos no son de los nuestros porque sí lo son son de los suyos y los han protegido no basta con eso

haber aprobado todas esas iniciativas parlamentarias que upyd ha defendido esas y otras muchas que se puedan poner en marcha ya digo hemos sufrido estamos sufriendo un crimen organizado

de las arcas públicas permitido por el bipartidismo esencialmente corrupto y por determinados partidos que han sustentado ese estado de cosas

y evidentemente en euskadi también ha habido casos de corrupción y además usted recientemente ha ofrecido al presidente del gobierno de españa un pacto de estado contra la corrupción

parece ser que usted este problema también le preocupa y por lo tanto hemos aprovechado esto que usted dijo para este debate y puesto que usted quiere ofrecer un pacto contra la corrupción y puesto que usted dice que está comprometido para luchar contra la corrupción queremos preguntarle efectivamente qué medidas concretas usted defendería nosotros plantearemos la moción correspondiente y obligaremos por tanto al resto de grupos a posicionarse sobres esas medidas específicas bastan ahora los lamentos no bastan las lagrimas de cocodrilo no vale con pedir perdón lo que hay que hacer es regenerar la democracia regenerar la democracia con medidas concretas yo le pregunto por esas medidas concretas que usted defendería

muy graves que se han producido en los últimos años en euskadi y que afectan

existe en todo el país y existe también en euskadi como usted sabe perfectamente gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea señor maneiro me podía haber

los que hagan referencia al partido nacionalista vasco aún cuando no sé si a mí me corresponde supuestamente que los haya si me corresponde a mí responderle en todo caso

intervención anterior ya ha anunciado una moción y volvemos a estar por lo tanto en el mismo ejercicio de darle explicaciones cuando usted ha presentado o ha anunciado la presentación de una moción mire yo ante esta cuestión sí le diré que la preocupación por la corrupción política

con responsabilidad institucional y política que la corrupción es una lacra que todas las personas presentes en este parlamento deseamos erradicar no me cabe ninguna duda señor maneiro y que somos muy conscientes de que esta no es solo una cuestión parlamentaria y legislativa

aquí podemos aprobar leyes como también se pueden aprobar y se han aprobado en el congreso de los diputados

somos conocedores de que es muy difícil erradicar la corrupción solo mediante la aprobación de leyes es necesario también actuar en el ámbito ejecutivo y judicial

adecuar el sistema judicial contamos también con herramientas jurídicas para abordar los problemas de corrupción y sin duda se pueden mejorar y ampliar

una policía integral y profesional al servicio de cuantas investigaciones o actuaciones para luchas contra la corrupción inicien jueces y fiscales

el compromiso del gobierno vasco estamos tomando medidas de prevención y control que sean capaces de eliminar cualquier tentación de corrupción e incluso de malas prácticas en la administración y me voy a referir por tanto a lo que el gobierno hace porque como usted ha dicho es cierto que me he mostrado muy preocupado

me pongo a disposición de quien quiera abordar una reflexión sobre un cambio de cultura política así lo dije he dicho también que debemos erradicar las malas prácticas que afectan a todos los órdenes de la vida a todos señor maneiro

un cambio en profundidad desde la base de los valores y porque es necesaria una nueva cultura que dignifique la vida política

también le digo que no estamos dispuestos a esperar cruzados de brazos hasta que estas reflexiones y cambios se puedan sustanciar así es que el gobierno actúa respondemos con hechos y hemos adquirido cuatro compromisos

las leyes la ley uno barra dos mil catorce de veintiséis de junio reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos

una ley muy exigente que quienes formamos parte de este gobierno estamos cumpliendo a rajatabla no por obligación sino por absoluta convicción señor maneiro

una ley ambiciosa y muy exigente en cuanto a los principios de la buena gobernanza que incorpora los principios de la transparencia la publicidad activa la evaluación de las políticas públicas segundo compromiso la transparencia y colaboración activa del gobierno el gobierno está cumpliendo estrictamente

todos y cada uno de los más de ochenta indicadores exigidos por transparencia internacional somos un gobierno y una comunidad ejemplar hemos conseguido

además de transparencia nuestro gobierno ha hecho gala de una exquisita colaboración activa con la justicia cuando ha planteado casos puntuales que ha sido necesario investigar y clarificar con celeridad sí señor maneiro lo hemos hecho precisamente para garantizar la presunción de inocencia y evitar que paguen justos por pecadores yo defiendo la presunción de inocencia y denuncio las situaciones en que no hay defensa posible ante una estigmatización pública sin juicio previo yo no comparto la estigmatización de la acción pública y política

el compromiso con un comportamiento ético el buen gobierno y la rendición de cuentas y hablo del código ético y de buen gobierno que ha sido firmado por todas las personas con responsabilidad pública de nuestro gobierno hablo de la comisión de ética pública creada por este gobierno

y que ha tomado decisiones relevantes tiene a su disposición porque son públicas las veintitrés resoluciones adoptadas hasta la fecha esto supone

esta comisión ha actuado ya con contundencia en casos que aunque jurídicamente correctos pero en los que se apreciaba una vulneración de los principios éticos que están recogidos en el código suscrito nos hemos encontrado por lo tanto con conductas impecables desde el punto de vista legal pero que han sido sancionadas por la propia comisión es importante subrayar que se trata de una comisión independiente que ha actuado y seguirá actuando con total garantía

una comisión abierta que cuenta con mecanismos para que cualquier persona pueda denunciar de forma anónima aquel comportamiento que considere contrario a la ética pública insisto creo en la transparencia y la rendición de cuentas públicas y este gobierno

y cuarto compromiso participación y libre acceso a la información pública

antes de que finalice el año la ciudadanía tendrá derecho a que la administración pública vasca le responda con rapidez a sus solicitudes de acceso a la información pública

un órgano independiente que nace para resolver los recursos que se planteen cuando las administraciones públicas no contesten a los requerimientos solicitados por la ciudadanía

y para finalizar sí quiero alertar sobre las estrategias de judicialización de la vida pública y política utilizar los tribunales para sembrar dudas

es una actitud que no comparto en absoluto respeto que se denuncien aquellas situaciones que se considere pueden ser constitutivas de delito pero no comparto que se utilice esa judicialización como instrumento de confrontación política no comparto esta actitud que está alimentando un sentimiento de cuestionamiento general del compromiso público y político ha hecho referencia usted a las medidas internas de upyd

las medidas internas que el resto de formaciones políticas con representación en esta cámara

las que el partido nacionalista vasco y seguro que antes que upyd adoptó ya usted apunta y exige la adopción de nuevas iniciativas por parte del gobierno mire nosotros estamos dispuestos a seguir haciéndolo pero si realmente como usted ha anunciado tiene usted algo que proponer yo

a que presente en esta cámara una iniciativa legislativa ha hecho mención a la presentación de una moción yo le animo a que lo debata y a que lo apruebe con los grupos parlamentarios

se puede hacer muchísimo más para acabar con la corrupción política para acabar con la corrupción política existente para hacer justicia y también para prevenirla muchas cosas que no se han hecho hasta ahora se pueden poner en marcha desde luego la actitud interna de cada uno de nosotros y de cada uno de los partidos políticos pero también sin duda cambios

que corresponderían al gobierno de españa se pueden hacer muchísimas cosas y yo considero que este gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente de hecho usted planteaba un pacto de estado o un acuerdo con el señor rajoy para impulsar determinadas medidas habría que

ha planteado hoy aquí me parece que son ciertamente escasas nosotros

ha sido básicamente para hacer justicia y para luchar contra la impunidad y yo creo que

la política y el comportamiento de tantos no son las acciones de upyd para acabar con la corrupción política o que upyd plantee unas cuantas querellas para hacer justicia sino la actitud de los corruptos y la actitud de los partidos políticos para defender a sus corruptos esto lo hemos visto durante largos años en el conjunto de españa lo hemos visto

políticos defendían a sus corruptos y no movían un dedo para acabar con esa impunidad por lo tanto se pueden hacer muchísimas cosas usted hablaba de la ertzaintza está usted seguro de que

entonces por qué se tardó tanto tiempo meses en hacer los informes que el juez pidió para resolver el caso de miguel efectivamente en euskadi ha habido muchos casos de corrupción es innegable el propio fiscal superior del país vasco dijo que en euskadi hay corrupción

y hemos tenido el caso de miguel hemos tenido el caso

determinadas irregularidades que han sido investigadas en distintos ayuntamientos y municipios de euskadi muchos de ellos gobernados por el partido nacionalista vasco en lemoa en lezama en alonsotegi en zalla en balmaseda

judiciales recientes y también en el pasado el caso jáuregui el caso ibarra el caso el caso de las máquinas tragaperras el caso urrutia o el caso barrika o el caso balenciaga o más recientemente el caso ibarzaharra

como la hay en otras comunidades autónomas españolas desde luego en otras comunidades autónomas puede haber muchísima más corrupción si se quiere pero aquí también la ha habido y por lo tanto

que además de cambiar la cultura política se pueden hacer muchas otras cosas más hay que poner en marcha por lo tanto medidas para luchar contra la corrupción y para prevenirla efectivamente nosotros a través de esta moción vamos a plantear batería de medidas muy concretas ya digo desde transparencia interna dentro de los partidos políticos a determinadas reformas legales para plantear primarias obligatorias en todos los partidos políticos o listas desbloqueadas en las distintas elecciones

de hoy todavía no existan puedan ponerse en marcha en fin

tantas otras por lo tanto es cuestión de voluntad política no conviene quitarle importancia a la corrupción durante demasiados años en españa se ha venido diciendo

y se ha demostrado que es el gran cáncer de nuestra democracia la corrupción política y la corrupción política no surge del cielo no viene del cielo se produce porque han fallado los controles y porque han fallado las leyes por lo tanto creo que

muchísimas cosas y nosotros las hemos defendido en el pasado los partidos políticos tradicionales han venido votándolas en contra

en el futuro es sin duda alguna la gran lacra de la democracia española por lo tanto no hay que rebajar su importancia

ápice es un problema que tenemos y hay que resolverlo

proponer medidas concretas que creo que pueden ser muy interesantes para avanzar en esa senda

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro este gobierno ha asumido un compromiso público he hablado de nuevas leyes aprobadas

de transparencia y de resultados algo que a usted le parece insuficiente y los resultados están ahí pero vamos a seguir adquiriendo nuevos compromisos

haremos efectivo el compromiso de responder en un plazo de quince días a las preguntas que nos pueda formular cualquier ciudadanos sobre cualquier materia

pueda fiscalizar la actuación del gobierno y demandar una respuesta extendemos este espacio de control parlamentario al conjunto de la ciudadanía a usted

que se ha generado en españa para fustigar a todo el mundo a todo el mundo mundial no solamente a este gobierno si no a todo el mundo mundial su única obsesión es quedar por encima del resto obviando las cuestiones que todo parlamentario toda parlamentaria vasca se compromete también como así he dicho en mi primera intervención en relación a lo que es el rechazo a la corrupción posible que

las administraciones vascas los cargos públicos los funcionarios y las funcionarias creo que somos fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos por eso mi planteamiento va más en orden al necesario cambio de cultura de cultura política

sana y transparente con valores yo admito que hay casos puntuales que necesitan ser esclarecidos y digo esclarecidos porque aún están muchos de ellos en fase de proceso judicial pero a día de hoy señor maneiro no hay ninguna sentencia condenatoria firme cuando la haya en lo que se refiera al gobierno vasco en lo que se refiera al gobierno vasco

y más allá de posibles casos puntuales que hayan podido darse en el pasado y que usted menciona y que pudieran darse en el futuro también porque ninguna sociedad

individuales incorrectas tenemos las manos limpias señor maneiro nosotros tenemos las manos limpias y me refiero a los casos que están juzgados y que puedan comprometer también a este gobierno usted ha hecho referencia

como si fuese de este gobierno oiga sitúe bien en el tiempo

y en relación a lo que es la justicia señor maneiro no sea usted honesto sea usted honesto con lo que es la gestión de los tiempos

sabe por qué tenemos las manos limpias básicamente por cuatro razones primero porque no encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales

porque en euskadi funciona la separación de poderes la separación de poderes a la que le apelo señor maneiro el poder legislativo controla y el poder judicial es un poder independiente y no condicionado por el gobierno pero en su caso señor maneiro usted dice que acude a la justicia para hacer justicia

justicia pues mire yo le pediría algo muy sencillo

denunciante instructor judicial fiscal juez y ejecutor de la sentencia porque usted aquí ha hablado de crimen organizado ha hablado de

periféricos usted fue quien decide actuar quien decide acudir a la justicia sinceramente no entiendo para qué lo hace si en cada oportunidad que tiene adelanta ya de manera pública una sentencia condenatoria por lo tanto le pido señor maneiro que no pretenda suplantar a los jueces no pretenda suplantar al juez a quien usted pueda recurrir espere su veredicto y tenga por seguro

en su caso en lo que a este gobierno corresponda este gobierno obrará en consecuencia además señor maneiro tenemos unos organismos de control institucional serios unos medios de comunicación activos y una sociedad vigilante y cuarto como ejemplo hemos desarrollado una política

aquí nos conocemos todas y todos señor maneiro y acabo por donde he comenzado en el tema de la corrupción nos va a encontrar activos vigilantes y abiertos

y lo hacemos con plena convicción y con la plena seguridad de que la máxima transparencia va a contribuir al logro del objetivo que compartimos

lehendakari hay ciertos indicadores que inquietan sobre la realidad de euskadi algunos de ellos están recogidos en el informe de la actividad emprendedora en euskadi publicado

con el aval de ustedes mismos del gobierno vasco como patrono del instituto y de la metodología internacional

ofrece en ese informe del año dos mil trece cuál es la situación del emprendimiento en euskadi

creame lehendakari no tengo ninguna intención de regodearme ni siquiera de echárselos en cara ni hacerle responsable directos de ellos pero que sí sirven para compartir con usted

y cómo afrontamos desde nuestra responsabilidad pública una realidad tan compleja como ineludible ante nosotros se abre un nuevo ciclo un nuevo escenario en el que muchos de los recursos y de las sinergias que hasta ahora nos han podido servir van a perder están perdiendo ya buena parte

de su eficacia y a los datos me remito sabiendo que hay un esfuerzo sabiendo que hay una realidad

los diferentes gobiernos han dotado de planes de emprendimiento a quienes quieren iniciar y buscar oportunidades de negocio sabiendo que también tenemos instrumentos como la ley de emprendedores que quiero recordar promovió el grupo parlamentario popular en

existen como digo esos instrumentos pero cabe preguntarse si realmente están siendo efectivos por qué porque la realidad es cambiante porque quizás esas medidas que hace dos tres cuatros años podían ser eficaces

que o no se están aplicando bien o no están dando resultados por qué por estos datos por los que le pregunto

la tasa de actividad emprendedora en euskadi esté en los índices más bajos de la última década cómo interpreta su gobierno que euskadi ocupe en dos mil trece

qué lectura hace su gobierno de este informe en el que se indica que al realizar una comparativa internacional

un escenario bastante desalentador cómo interpreta su gobierno que los negocios emprendedores

actividades de transformación es decir convertir las materias primas en productos elaborados apenas representen un trece por ciento del total y vaya disminuyendo

emprendedores con productos o servicios novedosos pasaran de representar el cuarenta coma cinco por ciento en dos mil doce a representar el treinta coma cinco

puntos menos cómo valora su gobierno que el citado informe no pudiera identificar ni un solo cliente exterior de los negocios emprendidos en euskadi en dos mil trece se lo decía al principio lehendakari no pretendo dibujar un panorama alarmante ni echar

y gestionar gestionar que el mundo es más competitivo que los viejos esquemas por los que pudimos mirarnos al ombligo vanagloriarnos de lo buenos que somos y lo bien que nos va no sirven en estos momentos y que para que sigamos siendo tan buenos y vivir tan bien tendremos que espabilar

y ser mucho más competitivos esta mañana mismo veíamos y

realidades que estamos viviendo en euskadi esas empresas que están marchándose que están buscando nuevas

esto qué quiere decir esto quiere decir que tenemos que hacer una reflexión que todo está cambiando que además esos discursos en los que se demonizaba al empresario

obsoletos hay que preguntarse qué está pasando por qué está ocurriendo todo esto más allá de la respuesta del gobierno de decir nos oponemos al cierre

saber qué es lo que está ocurriendo porque no estamos siendo capaces de retener esas empresas que son las que generan

quizás durante demasiado tiempo se ha asistido de una manera pasiva a esos discursos en los que se presentaba al empresario al emprendedor

personaje negativo para la sociedad y quizás esté en nuestra parte en aquellos que sí que apostamos por los emprendedores que sí sabemos que el empleo se genera a través de los empresarios quizás esté parte de nuestra culpa de no haber estado en una acción más positiva poniendo en valor a los empresarios

con todo rigor es porque nos preocupa la adaptación de euskadi a realidades nuevas y porque entre todos tenemos la obligación de trabajar por modernizar euskadi

viejos esquemas viejas recetas que ya no sirven y solo así podremos recuperar la esencia innovadora de una sociedad que no puede dejar de serlo

en esta crisis con cierta ventaja gracias a la capacidad de respuesta pero poco a poco la estamos perdiendo y estos datos como otros relacionados con la actividad económica de nuestro tejido industrial

nuestra debilidad estructural en cuanto a una población demasiado envejecida y con pocos índices de natalidad nos obligan

a transformar y modernizar euskadi para poder enfrentarnos con más competencia a un mundo ferozmente competitivo a un entorno más complejo y difícil

al de aquella crisis que es muy distinta a la actual y que supimos superar con éxito

y así de cambiante está siendo la era global y las recetas de entonces

la transformación es obligada la transformación de nuestras estructuras y la reestructuración de nuestros sectores de producción son en este momento una obligación y es su obligación lehendakari transformar para crear valor como lo hacen los empresarios vascos

innovar en un país que necesita transformar profundamente su estructura social política y económica su sociedad sus empresas sus emprendedores todos hemos vivido procesos de transformación personales también los países necesitamos de innovación global una transformación social y económica y repensar euskadi el nuevo modelo que necesita euskadi es un modelo de transformación social y económico

esto es lo que estamos planteando y este es el objeto de esta interpelación saber que solo podremos afrontar un futuro global desde un presente y una mentalidad global también en la política es el motivo lehendakari

y quisiéramos saber desde mi grupo sus interpretaciones cuál es la interpretación que usted hace de esta situación para vislumbrar cuál es su modelo económico y social para la euskadi del siglo veintiuno muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora quiroga yo puedo compartir con usted muchas de las reflexiones que usted ha planteado en su intervención

creo que son muy rebatibles algunos de los datos que usted ha aportado pero compartiendo la reflexión también hay alguna parte de su intervención

a titulares de determinadas personas que han intervenido también en reflexiones en debates y que han tenido

mire la primera constatación que tengo que hacer es que el gobierno más allá de propósitos tiene programas y tiene planes de actuación en marcha y le recuerdo que este gobierno toma posesión

y ya hemos pasado sí la etapa de los propósitos el primer escalón de esta etapa lo superamos el día dos de julio del año dos mil trece y no ha pasado más que un año y medio ese día firmamos el acuerdo marco de colaboración para el desarrollo de un sistema vasco de emprendimiento dos mil dieciséis

gobernada por el partido popular el segundo escalón lo superamos el veintiuno de julio de este año veintiuno de julio de dos mil catorce día en que aprobamos el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora hace cinco meses y este plan fue remitido al parlamento y fue aprobado por este parlamento este plan fue presentado públicamente y además conjuntamente

y también nuevamente con las tres diputaciones forales en el mismo participan además del gobierno vasco cuatro departamentos del propio gobierno vasco el tercer escalón lo superamos con la aprobación del presupuesto total asociado al plan de apoyo para el presente ejercicio dos mil catorce con una dotación de setenta y uno millónes trescientos veintiséis mil treinta y nueve euros

en el mismo por lo tanto los propósitos del gobierno son claros y los hemos compartido con las tres diputaciones forales los estamos compartiendo usted ha presentado

monitor y estos datos hacen referencia a la baja tasa de emprendimiento de la comunidad autónoma en relación

y yo le digo que es un dato cierto pero usted ha leído determinados datos determinados datos que yo intento rebatirle me va a permitir que le lea algunos más o algunas más referencias de ese mismo informe que a usted casualmente

y le cito textualmente la tasa de actividad emprendedora en el país vasco refleja un retroceso respecto al dos mil doce pero el número de personas emprendedoras

muestra una gran fortaleza situando a la comunidad autónoma del país vasco en cuarta posición respecto al resto de países de la unión europea lo dice el informe la comunidad autónoma también dice el informe se ubicó por encima de otras comunidades autónomas

que ofrecía un producto o servicio nuevo para todos los clientes dice también el informe el capital semilla de los nuevos proyectos de negocio en euskadi se sitúa

lo dice el mismo informe al que usted hace referencia y dice también el informe al realizar una valoración comparativa de las valoraciones de las personas

españolas y europeas entrevistadas se observa que las condiciones del entorno vasco que destacan son los programas gubernamentales la educación y las políticas de apoyo y también incorporo en los programas gubernamentales aquellos que son compartidos por el conjunto de las administraciones públicas vascas estas cuatro frases son textuales señora quiroga no he tenido que ir a buscarlas en lugares recónditos del informe porque se pueden leer en un lugar muy destacado

de resumen ejecutivo del mismo que curiosamente está al principio del informe en cualquier caso usted se aferra a determinados datos y yo le voy a responder también con tres datos primero un dato de contexto para acercarnos a esta cuestión con la debida prudencia las sociedades con altos niveles de desarrollo económico y bienestar menor actividad emprendedora y viceversa la realidad es que las tasas de emprendimiento en países como alemania dinamarca suecia o japón son bajas como en euskadi y por el contrario las tasas más elevadas del mundo se encuentran

segundo un dato para analizar el efecto real del emprendimiento está claro que el objetivo de actividad emprendedora es facilitar la creación de nuevas empresas y negocios pues muy bien

se crearon en euskadi más empresas que en dos mil nueve dos mil diez

y un dato adicional en el mes de junio de este año dos mil catorce euskadi llegó a situarse a la cabeza del estado en cuanto a creación de empresas

para dar a conocer la dimensión de los resultados del emprendimiento admito que no solo es importante crear nuevas empresas

la dimensión de las mismas pues bien en este mismo año dos mil trece el año pasado que a usted le ha servido como referencia las sociedades constituidas en euskadi alcanzaron un capital medio suscrito de ciento ocho mil euros la media de las sociedades en españa fue

yo le pido por lo tanto en definitiva una lectura más completa y más contextualizada en relación a la materia del emprendimiento e insisto compromiso compartido señora quiroga y concertado para su impulso aquí en euskadi en la comunidad autónoma del país vasco beraz argi dugu gobernu batek

quizás el haber puesto de manifiesto esos datos han hecho que usted salga a la defensiva en una interpelación y se lo he dicho en mi primera intervención que no era para que usted

para decir lo mucho que están haciendo sino poner de manifiesto la realidad ante la que estamos porque estamos viendo cómo hay empresas que están marchándose y que están desapareciendo y eso genera desempleo

de nuevo esos puestos de trabajo que no van a ser de la misma manera y creo que usted y yo eso lo compartimos porque lo hemos hablado y ese diagnostico lo compartimos que la generación de empleo va a ser más lenta y que va a ser probablemente a través de pequeñas microempresas y que esa es la transformación

y en la que creo que también este gobierno vasco y las instituciones tienen que estar atentas usted me decía es verdad que en el resto

en otros países o que en el resto de las comunidades autónomas se generen más empresas

efectivamente creo que eso es una de las fortalezas que tiene el efecto o el hecho

sino porque hay una oportunidad real de negocio esa es la fortaleza que tiene el fenómeno del emprendimiento en euskadi respecto a otras zonas

que no podemos despreciar por qué porque el emprendimiento que se hace en euskadi

en el hecho del emprendimiento que haya muchas sino que realmente esas sean obedezcan a oportunidades de negocio que sobrevivan y que realmente

de una base que es importante pero que no es a veces compartida por todos los grupos parlamentarios o por todas las opciones ideológicas es el hecho de partir de la idea de que aquí en euskadi se crea empleo a través de las empresas

ahora les tenemos que llamar emprendedores por aquello de generar

pero es lo mismo es decir son las empresas las que crean empleo si tenemos eso claro yo creo que tenemos que desarrollar toda una política de transformación

porque como le decía una de las preguntas que aquí nos estamos planteando

y estamos viendo como se están cayendo algunas estructuras estamos viendo como algunas empresas se están marchando y hay que decirlo por la conflictividad laboral que tenemos

que ahora no están funcionando y que lo que están haciendo es provocar que algunas empresas se tengan que marchar

para que sus proyectos salgan adelante y esto está ocurriendo y hay que decirlo y eso apela a la responsabilidad que tenemos cada uno desde sus ámbitos para tomarnos en serio el futuro de euskadi y a mí me llama la atención cómo en este parlamento somos capaces de dedicar mucho tiempo

nuestra relación con el resto de españa cuál es nuestra relación cómo tiene que ser ese ámbito jurídico si tenemos que reformar o no el estatuto pero no somos capaces de dedicar tiempo a cuál debe ser el futuro de crecimiento de euskadi cómo puede ser ese progreso y me parece que además es uno de los principales problemas

la creación de empleo y el futuro y el desarrollo económico de esta sociedad mire usted me dice que este gobierno tiene un compromiso claro y aquí me lo estaba diciendo

no están funcionando o su gobierno no las está aplicando yo me voy a la ejecución presupuestaria lehendakari me voy a la ejecución presupuestaria de esas políticas de emprendedores

desde el departamento de lanbide hasta el departamento de emprendimiento es que

se haya ejecutado en el tema de emprendimiento y por eso le décimos lehendakari

de las partidas que estemos viendo apoyo a emprendedores innovadoras de empleo juvenil innovadoras para el emprendizaje juvenil no tienen una ejecución presupuestaria

es precisamente que aquí en el parlamento podamos abrir esa reflexión sobre cuál es el futuro de euskadi
en materia de emprendimiento gracias eskerrik asko lehendakari jauna zurea da hitza

insisto me preocupa el emprendimiento y al gobierno le ocupa impulsarlo y no es que con los datos que yo le he ofrecido haya querido ponerme a la defensiva en cualquier caso usted no ha rebatido ninguno de los datos que yo le he ofrecido pero

la necesidad de aumentar la tasa de emprendimiento en el país vasco tampoco quiero expresar la falta de interés de este gobierno por apoyar a las personas

lo que quiero decir es que no basta solo con preocuparse preocuparse es muy sencillo

al que he hecho referencia y además en cualquier caso insisto el gobierno vasco y las tres diputaciones forales

tenemos en marcha un plan de actuación conjunta en esta materia que el plan se estructura y usted plantea una iniciativa pues mire yo le voy a explicar

a pesar de que gobierne en la diputación foral de araba en un plan conjunto con las otras dos diputaciones y con el gobierno vasco el plan se estructura en cinco ámbitos de actuación el apoyo al desarrollo de ideas y nuevas iniciativas el apoyo al crecimiento y consolidación de las nuevas empresas el fomento de la cultura y los valores del emprendimiento el apoyo al intraemprendimiento en el seno de las empresas ya existentes

de la eficacia del conjunto del sistema de emprendimiento vasco y el plan no se queda solo en declaraciones identifica ciento diez programas de actuación identifica

un total de sesenta y dos millónes de euros en dos mil trece y setenta y dos millónes en dos mil catorce sinceramente considero que es una base de trabajo excelente que todos debemos poner en valor antes de reclamar nuevas medidas e iniciativas

en marcha realmente cree usted que sin haberse cumplido un año de su aprobación nuestra obsesión debe ser inventarnos nuevas medidas

a los responsables de la diputación foral de araba que participan en este plan conjunto creo que más bien es momento de simplificar y de ofrecer ventanillas directas

no de marear a las personas emprendedoras de este país con nuevas iniciativas de apoyo planak ehun eta hamar jardun programa identifikatzen ditu

aurrikusita daude gazteen enplegua sustatzeko en definitiva señora quiroga estamos de acuerdo en impulsar el emprendimiento estamos de acuerdo

en incentivar la reactivación económica y el empleo pero pongamos todo en sus justos términos reconozcamos que el gobierno y las instituciones insisto no solo el gobierno vasco

estamos poniendo encima de la mesa las medidas necesarias para mejorar el entorno

las que tienen que tomar su propia decisión deseamos volver a recuperar el espíritu de emprendimiento y valentía que ha caracterizado siempre a nuestro país pero de una forma conjunta entre el gobierno y las diputaciones y con datos alentadores

constatar que los propios empresarios las propias organizaciones patronales empresariales como es el caso de confebask

días que hay una creación de empresas también en la comunidad autónoma del país vasco cuando hagamos

lo basemos también en datos objetivos incluso los de las propias organizaciones patronales empresariales

y también en los indicadores de la evolución de la economía y de las propias empresas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el parlamento insta al gobierno a solicitar nada más aprobarse esta proposición no de ley una reunión a los consejeros delegados de las empresas iberdrola y endesa propietarias de la central de garoña a fin de trasladarles el contenido de la proposición no de ley y de darles a conocer la opinión contraria a la reapertura de garoña de la mayoría política de la comunidad autónoma vasca representada

egun hartan otsailean beste akordio bat hartu zen ganbera honetan el parlamento insta al gobierno a utilizar todos sus recursos institucionales y jurídicos para que la central nuclear de garoña

aurtengo ekainean beste akordio bat el parlamento vasco solicitará el amparo de la comisión europea ante una posible reapertura de la central nuclear

tuvo lugar una reunión entre el departamento de desarrollo económico y competitividad con nuclenor el día treinta y uno de marzo de dos mil catorce con el fin de darles a conocer la voluntad de la mayoría política de esta cámara y el mandato que se nos dio

que no había ninguna decisión adoptada con relación a la solicitud de reapertura de la central y que se estaban analizando los diversos impactos que podía tener derivados de las últimos modificaciones legislativas no olvidemos que el cierre se debió a razones

dado que la central se encuentra por motivos técnicos ya bastante envejecida y fuera de uso pero fueron motivos económicos los que obligaron a su cierre o su parada temporal

los acontecimientos sobrevenidos desde esa reunión y por supuesto desde mi última comparecencia desde la última vez que hablé en esta cámara respecto a la central de santa maría de garoña

el pasado mes de mayo nuclenor solicitó a pesar de que nos dijo que no tenía ninguna decisión adoptada solicitó formalmente

la renovación hasta dos mil treinta y uno como usted decía de la autorización para explotar santa maría de garoña por qué hasta dos mil treinta y uno es decir diecisiete años más

que la tecnología de explotación de esa planta derivada de una tecnología estadounidense son sesenta años los que habitualmente tienen en marcha ese tipo de centrales a pesar de que nosotros consideramos que la vida útil de esa instalación a finalizado desde luego

dado que la propia empresa solicita que ese es el período que debe tener dadas las condiciones técnicas esos son sus razonamientos el gobierno del estado

nuclear que es un informe preceptivo no vinculante si este informe fuera negativo obligaría

quedando la decisión en manos del ministerio es decir insisto es preceptivo

obligaría al cierre si el ministerio así lo decide no solamente porque el consejo de seguridad nuclear lo diga hay que destacar que este consejo de seguridad nuclear

está elaborando el informe correspondiente y ha solicitado a través de una instrucción técnica complementaria de uno de agosto la obligación de que se cumplan una serie de requisitos adicionales

nuclenor remitió el pasado treinta de septiembre al consejo de seguridad nuclear

no cabe duda de que es el informe que debe emitir el consejo de seguridad nuclear y la decisión en base a ese último requerimiento que se ha solicitado

beste batzar batzuk publiko egiten dira galán ratifica a urkullu el compromiso de iberdrola con el país vasco

zergatik ez argazki bat nuclenorrekin el gobierno vasco va a solicitar

que cumpla lo que la mayoría social y política de este país opina sobre la reapertura de garoña

bi mila hamabiko abenduaren hogeita hamaika el gobierno vasco pide a bolivia que actúe con transparencia y justicia con iberdrola

para meterse en un tema de bolivia pero trayendo la pregunta al tema que nos trae aquí por qué no un titular de un comunicado del gobierno vasco que diga

con la ciudadanía vasca por qué no un titular y un comunicado en los mismos términos por qué se meten ustedes en una cuestión de bolivia cuando le expropian a iberdrola eta hor bai irmotasun askorekin

y sí quiero decirle que desde luego este parlamento ha tenido una postura clara y el gobierno tiene la misma postura clara y la hemos transmitido en más de una ocasión

porque el efecto que el cierre de esa central nuclear pueda tener sobre el empleo de las personas que están trabajando ahí lo que puede afectar sobre el territorio histórico de álava hemos sido perfectamente conscientes de lo que ocurría y se ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión

hay que poner en marcha un plan de empleo hemos sido pioneros en ponerlo también luego compromiso

para paliar los efectos que ese cierre pueda tener beraz